muchas gracias presidente del parlamento brevemente porque quiero dejar

en relación con la proposición de ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades yo básicamente lo que quiero poner en valor es el buen y profundo trabajo realizado por todos los grupos en la ponencia durante este último año que ha sido un trabajo

caracterizado por el diálogo y por el acuerdo que se han incorporado

enmiendas de todos los grupos políticos también enmiendas planteadas inicialmente por upyd y que finalmente en el caso de upyd quedan pendientes de debate luego se procederá

un número concreto de quince enmiendas que luego defenderé creo que podemos estar relativamente satisfechos con el contenido

quince enmiendas que lo que pretenden todavía siguen pretendiendo es mejorar el contenido de esta ley creo que podemos sentirnos satisfechos y que en general hemos alcanzado los objetivos que inicialmente nos proponíamos en la exposición de motivos y en el artículo uno

o los objetivos de esta ley se señalan también los principios generales que rigen el código de conducta de los cargos públicos se regla también el conflicto de intereses y se establece el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos y además se señalan las obligaciones de los cargos públicos

para el resto del pleno y también para defender las enmiendas que todavía vamos a defender en relación a esta cuestión después únicamente agradecer

y que efectivamente tenemos creo una buena ley y que nos podemos sentir relativamente satisfechos gracias eskerrik asko maneiro jauna hurrengoa

señores consejeros y consejeras muy brevemente también para en la línea de lo expresado por el señor maneiro compartir una muy breve reflexión

ahora que quienes nos dedicamos a la política y el ejercicio mismo de la política cuenta con un alto grado digámoslo de insatisfacción entre los ciudadanos

conviene resaltar cuando somos capaces de ponernos de acuerdo para introducir elementos de control sobre la función pública

compartido por la totalidad de los grupos parlamentarios representados en esta cámara lo cual ya es una buena noticia sino que además ese ha sido el espíritu ese ha sido la voluntad y ese ha sido el ánimo

de toda la ponencia creo que se ha desprendido de los trabajos y del trabajo realizado en la misma una voluntad

de estos debates pero insisto una voluntad manifestada y expresada y demostrada con el texto que hoy se somete a consideración

pero es mucho mejor que esa voluntad se concrete y esa voluntad se plasme sobre blanco esta proposición de ley de código de conducta y de los conflictos de intereses a los cargos públicos garantiza fundamentalmente elementos de transparencia

de los cargos y algo también fundamental como es la eficacia y la dedicación de los mismos en el ejercicio de su función por lo tanto lo que creemos es que esta es una medida más que debe ir acompañada obviamente de otras muchas pero es una medida más que

la confianza de la sociedad en quienes ejercen también en quienes ejercemos pero

algo tan importante para la sociedad como es la función pública nosotros hemos las enmiendas que habíamos reservado para el pleno entendiendo que habían sido suficientemente debatidas en comisión y por lo tanto mostrar una vez más nuestra satisfacción

de esta legislatura y estamos ya en el ecuador del mandato de este gobierno y quiero recordar que tres de esas cuatro leyes que vamos a llevar aprobadas hoy han sido a propuesta de los grupos de la oposición

del grupo socialista pero hoy queremos hablar de los beneficios y de lo que significa esta ley en cuanto a transparencia y control sobre la gestión de lo público y el resultado además hay que reseñar que es de un consenso muy amplio

y quiero además poner en valor la capacidad de acuerdo de todos los grupos que han intervenido en esta ley y tenemos algo bueno tenemos un instrumento mejor tenemos más controles y tenemos fuerza legal para impedir que nadie busque en la política beneficios económicos y lo tenemos además compartiendo ese amplio consenso que mencionaba antes y en este año de trabajo más allá de las diferencias creo que hemos encontrado un punto de conexión entre todos los miembros de la ponencia y es que queremos más controles pero no queremos poner vallas

cualquier ciudadano pueda acceder a la política y para ello además he repasado la ficha de los setenta y cinco parlamentarios y parlamentarias que nos sentamos en esta cámara

venimos de orígenes muy distintos hay funcionarios hay profesionales liberales autónomos baserritarras en fin trabajadores por cuenta ajena de todo y miramos este parlamento y vemos a la ciudadanía que tenemos ahí fuera

también sean así plurales gentes que dejen de dedicarse a sus trabajos habituales

de lo público en beneficio de la ciudadanía y que luego puedan regresar al lugar de donde vinieron a mediodía este pleno parará parará para recordar a enrique casas que era un físico con un compromiso político al que los asesinos cercenaron su vida y en unos meses

pediatra también con un gran compromiso político por este país

le mataron la vida a tiros y sus placas estarán junto a las de gregorio ordóñez

que decidió defender los intereses de los ciudadanos y los asesinos cortaron su voz y también estarán junto a la placa de fernando buesa un abogado que dejó su despacho para poner orden en la educación pública en este país que integró a las ikastolas y que tenía una profunda vocación de servicio público

fue reventada por unos asesinos que quisieron impedir que hoy estuviéramos aquí gentes diversas de orígenes diversos representando a una ciudadanía diversa
y debemos de alegrarnos de haber ganado de estar así y de poder seguir garantizando que esto sea así nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia andrea

ezin ukatu ordea aurrerapauso inportantea dela eta hori da balioan jarri behar duguna desde nuestro grupo queremos destacar la importancia de esta ley

de los ciudadanos en sus instituciones y en la política que dicho sea de paso buena falta nos hace los casos de corrupción que se han producido

nula pero no es justo que las malas prácticas de unos pocos pongan en duda el comportamiento de muchas personas que ejercemos funciones públicas como sería terriblemente injusto por ejemplo mantener que todos los deportistas se dopan pues en política lo mismo no todos los que nos dedicamos a este noble oficio somos unos jetas y unos caraduras a través de la nueva ley

al mayor número de personas que ejercen funciones en puestos de responsabilidad política y yo me atrevo a decir que creo que no se nos ha escapado ninguno la ley introduce además una novedad importante y establece con rango de ley todo un

actuación que deben observar los cargos públicos y asimilados en el ejercicio de sus funciones

en la ley es riguroso en consonancia con las demandas de la ciudadanía porque el incumplimiento del código se castiga con la destitución del cargo público aunque como saben ustedes esto no es novedad ya que los incumplimientos del código éticoaprobado por el gobierno del lehendakari urkullu también

la dedicación exclusiva y la retribución única la prohibición de realizar determinadas actividades privadas durante los dos años posteriores al cese

y derechos patrimoniales de los cargos públicos aspectos todos ellos que están encaminados a garantizar la transparencia la imparcialidad la eficacia y la dedicación de quienes desempeñan cargos públicos y que sin duda contribuirán a acercarnos a la ciudadanía y a recuperar su confianza eta nik ere bukatu

y la cotización a la seguridad social para luego tener un desempleo en el que los socialistas estamos totalmente de acuerdo es verdad que en el trabajo de la ponencia lo tratamos y yo creo que se podría obtener una mayoría en la cámara en torno a esta cuestión pero consideramos que no era el lugar adecuado legislativamente hablando el meterlo

de un código de conducta de conductas éticas de un régimen de incompatibilidades y sin embargo en los próximos meses espero aunque debería de haber entrado ya debería de estar de entrar en esta cámara la ley de administración pública que en su seno por lo que hemos oído

ese régimen especial que tienen los altos cargos del gobierno cuando

al que volver entonces ahí en ese momento creo que es cuando corresponderá debatir en la cámara en la ponencia y acordar si es posible el cambio y la modificación a la cotización al desempleo de los altos cargos en cuanto a la otra enmienda de no compatibilizar en absoluta ni el cargo de concejal ni el cargo del alcalde de menos de cincuenta mil habitantes con un cargo de gestión del gobierno

poner en conocimiento de la cámara lo que dice exactamente el artículo que vamos a aprobar hoy

permite la excepcionalidad en esos casos porque resalta claramente que podrán compatibilizar su actividad con la de miembro electo de las entidades locales

salvo que en la entidad local tengan una dedicación exclusiva claramente hay una incompatibilidad o una dedicación fija a tiempo parcial

eso ya lo va a marcar el artículo entonces una persona si se dedica exclusivamente a alcalde o a concejal no puede estar en el gobierno y si además si no es dedicación exclusiva es una dedicación parcial fija tampoco

pero pueden darse algunas situaciones de tránsito en fin yo creo que esta ley lo que permite es flexibilizar de alguna manera pero desde luego respetando

necesitan una dedicación exclusiva y también el ayuntamiento y por lo tanto yo creo que el artículo casa ese difícil círculo

yo creo que es el espíritu de lo que fue la enmienda de su grupo y lo que usted ha defendido hoy aquí entonces es por eso por lo que creemos que es mejor el texto del dictamen del informe del dictamen que hoy traemos a la cámara

espero pronto que venga a la cámara la ley de administración pública eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea

a ver el artículo en el que se pretendía recoger el tema del desempleo es un artículo que lleva como título la retribución única y los cuatro párrafos que tiene ese artículo en su interior van dedicados a tratar ese tema precisamente que solo se puede percibir una única retribución económica independientemente del número de cargos o designaciones que ocupemos los cargos públicos vascos

principalmente y no trata en absoluto es decir los cargos públicos incluidos en el ámbito de aplicación no podrán percibir más de una retribución con cargo a los efectos de esta ley

correspondiente al puesto de trabajo como consecuencia del nombramiento designación no tendrán la consideración de retribución las cantidades que perciban en concepto de indemnización

puede ser un viaje o lo que fuera y por último el último es también de pura lógica es decir si el gobierno designara o nombrara a alguna persona para labores de gobierno y esta estuviera cobrando una pensión de jubilación

luego yo creo que en el trabajo que hemos decidido hacer en la ponencia de no introducir en este artículo y en esta ley el tema del desempleo creo que está bien vamos a ver cómo trae el gobierno en esa otra ley

todo el tema de las retribuciones de los altos cargos vamos a verlo pero tendremos tiempo para mejorarlo y tratar de hacer una cosa bien hecha en ese aspecto concreto

yo me he quedado muy satisfecha de este artículo queda pendiente esa otra tarea pero creo que la redacción de este artículo es muy completa y va destinada al tema de una única retribución por persona independientemente del número de cargos que le toque ostentar que tampoco son muchos gracias

sin perjuicio del régimen jurídico privativo para regular la organización régimen y funcionamiento de sus propias instituciones y órganos forales

de relaciones entre las instituciones comunes y los órganos forales de los territorios históricos y a los artículos tres veinticuatro punto dos veinticinco punto uno treinta y siete punto uno dos

del estatuto de autonomía del país vasco los territorios históricos tendrán en cuenta

que rigen el código de conducta de los cargos públicos gure ustez indarrean dagoen legediaren arabera lurralde historikoek duten

andrea para tratar de explicar o situar la cuestión porque en realidad el partido nacionalista vasco que en un principio presentó una enmienda de supresión de las disposiciones adicionales de la propuesta original de los socialistas luego ha llegado a una posición en la que en el espíritu trata de recoger lo mismo es decir que las instituciones forales

a la ley que hoy vamos a aprobar en esta cámara y yo la verdad es que le agradezco también el esfuerzo de aproximación al espíritu que se ha hecho desde el grupo nacionalistas vascos pero a mí me gustaría leerles un texto

y dice el estatuto de autonomía ha dotado a euskadi de un sistema institucional nuevo al establecer unos órganos de autogobierno comunes entre los que destaca particularmente el parlamento vasco

expresa la supremacía que en todo estado de derecho representa la ley y políticamente la voluntad del pueblo vasco y esos somos nosotros los que nos sentamos aquí

y seguramente igual en el turno de la réplica utilizará usted el núcleo intangible de la foralidad que en este país es casi para algunos como mencionar en la iglesia pues la santísima trinidad y su misterio que ocasiona cismas pero yo creo que aquí de lo que se trata del código de conducta del cargo público en general en todo euskadi y de su régimen de incompatibilidades y eso no pertenece al ámbito de la tradición

y respetuosa con el régimen establecido en la ley de territorios históricos porque como parlamento que somos lo que no vamos a hacer es incumplir las leyes de este parlamento y no invade

y este texto que les he leído pertenece a la exposición de motivos de la propia ley de territorios históricos y el texto de la ley que aprobamos hoy yo quiero ponerlo en valor

de conductas será el establecido por los órganos forales es decir ellos establecen su código de conducta y su régimen de incompatibilidades en su normativa propia no obstante

de actuación y conducta a las reglas relativas al conflicto de intereses y en los términos que especifique su normativa por lo tanto qué estamos diciendo que este parlamento tiene capacidad

éticos comunes a todos los que nos dedicamos a la cosa pública en euskadi en los diferentes niveles administrativos a mí me parece que es de mucho sentido común como lo fue en la redacción por parte de los padres del estatuto de autonomía y yo creo que además en la voluntad del legislador de la lth tampoco estaba ese afán expansivo

otorgar siempre por lo tanto aquí de lo que se trata y a mí creo que además en la legislatura pasada también hay otra ley que se aprobó con una redacción igual de cuidadosa y que además no ocasionó que las diputaciones forales

que es la ley de publicidad institucional es avanzar

que la propia ley de territorios históricos señala que constituye euskadi y sus instituciones comunes con unas competencias que tenemos la obligación los que aquí nos sentamos de poner en valor y de desarrollar respetando las diputaciones forales forales que son y las capacidades que estas tienen yo creo que el artículo es perfectamente exquisito tanto en su párrafo primero

las especificidades como digo y sobre todo la capacidad de autoorganización que suele ser además el argumento que siempre se utiliza

egun on berriro ere yo diría que este punto ha sido precisamente el nudo gordiano de esta ley ha sido el punto de no encuentro

sobre él porque nos lleva a una problemática que es mucho más amplia de lo que compete al articulado de esta ley en el fondo estamos hablando de la lth es un debate pendiente es un debate que habrá que acometer antes o más tarde

ante esta situación nuestro grupo va a apoyar el texto original y no va a apoyar la enmienda presentada por el partido nacionalista vasco pero dejando claro

es algo que en este grupo se defiende y que este debate quizás no era ahora el momento de plantear este debate queremos hacer con esta ley una visión conjunta del país y por eso vamos a aprobar el texto original y

a dejar pendiente una discusión que realmente nos va a obligar a todos los grupos a tomar posturas importantes en un tema

que ya está clamando que empecemos a tratarlo

en principio yo al leer la enmienda del partido nacionalista empieza con una frase que un jurista me explicó

sin perjuicio siempre es con perjuicio siempre

va a afectar e inmediatamente veo que a lo que afecta es precisamente

que en principio quiero pensar

aunque no lo sea todavía el embrión de unas instituciones de país más amplias que tenemos que defender y apoyar sin menoscabar en absoluto o sin perjuicio aunque

las competencias y las atribuciones que tienen adjudicados los territorios forales

daukadan de lo que se trata en definitiva

otro de los argumentos de fondo es que el lehendakari su gobierno las instituciones vascas ejercen los poderes del estado en la comunidad autónoma vasca por lo tanto desde el punto de vista

de función pública pueden ejercer esas reglas básicas esos principios básicos que inspiren los aspectos organizativos y de funcionamiento

por lo tanto creemos que no existe ningún problema me parece una buena noticia que

su código de conducta y su régimen de incompatibilidades pero entiendo que no tiene que haber ningún problema porque los principios y valores que entiendo que deben de ser compartidos y serán compartidos por todos seguramente

qué hay de malo que estén en una ley emanada por el este parlamento qué hay en contra de

de los cargos públicos de los principios de conducta que hablen de serán responsables de sus decisiones y acciones deberán someterse a los controles que resulten pertinentes respetarán los principios de imparcialidad ecuanimidad objetividad son principios por todos compartidos por lo tanto es importante que nosotros

como considere mejor porque son quienes mejor conocen sus casas

es por lo que creemos que la ley que hoy se aprueba además de ser una buena ley porque profundiza en el régimen de incompatibilidades en la transparencia en el control público del ejercicio de las funciones públicas

respetando por supuesto la ley de territorios históricos en su redacción actual

que la anima así pues no voy a intervenir más largo porque realmente de este tema ya debatimos en la ponencia las posiciones yo creo que están claras

debatiremos también seguramente con alguna otra ley cuestiones relacionadas con este aspecto que

sí muchas gracias presidenta nosotros tenemos pendientes

que no las hemos mantenido digamos que por cabezonería sino que simplemente son las quince enmiendas que quedaron pendientes e incluso de votarse en la última

alguna otra fue retirada finalmente pero estas quince sí que hemos decidido mantenerlas ciertamente pretenden un mayor nivel de exigencia del cargo público puesto que la ley que se va a aprobar es un avance pero en nuestra opinión podía ser más avanzada podía considerarse que en algunos aspectos

y de ahí que queramos mantener todas estas enmiendas la primera de ellas es relativa al ámbito de aplicación

públicos de las diputaciones forales de los territorios históricos y de su sector público y también a los cargos públicos de las entidades locales del país vasco y de su sector público aunque sabemos perfectamente que a estos les afecta la ley de bases de régimen local se nos dirá que esta propuesta contraviene la legalidad vigente y

no tiene en cuenta la distribución de competencias bien es correcto pero en todo caso nosotros la mantenemos porque nos parece razonable nos parece razonable que no solamente afecten a los cargos públicos de las diputaciones forales de los territorios históricos

digamos los principios generales de esta ley sino que la propia ley también pudiera afectarles efectivamente esto no va a ser posible en un breve espacio de tiempo pero esperamos que más pronto que tarde

pueda ser así porque querrá decir que el entramado institucional vasco se ha racionalizado y nos hemos modernizado internamente la segunda de las enmiendas planteadas hace referencia a los derechos lingüísticos de los ciudadanos

original lo que se dice es que en el ejercicio de su actividad los cargos públicos garantizarán el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos

y fomentando su uso digamos que estamos de acuerdo con la primera parte de esta afirmación la segunda parte nos parece un exceso nosotros pensamos que efectivamente en el ejercicio de su actividad los cargos públicos deben garantizar

efectivamente pensamos que esto debe hacerlo pero decir que además su labor debe ser fomentar su uso o impulsar la normalización del euskera

sobre esto ya se debatió y efectivamente creo recordar que ningún grupo salvo el partido popular

enmienda la enmienda número nueve la enmienda número nueve hace referencia al deber de abstención e inhibición se propone en el texto original que no intervendrá en el conocimiento o decisión de

a intereses de empresas sociedades o entidades de cuyos órganos de dirección o de gobierno hayan formado parte en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público etcétera nosotros proponemos ampliar de dos años a cinco años

en este asunto esto es lo que propone nuestra enmienda número nueve ampliar de dos a cinco años cosa que también en otros artículos de la ley hemos

la enmienda número diez lo que propone con ella lo que proponemos es que la retribución máxima de un cargo público sea la de un viceconsejero

apenas se debatió este asunto y no se me dieron razones o al menos

rechazar finalmente esta enmienda proponíamos en todo caso que la retribución máxima sea la de un viceconsejero del gobierno vasco

once proponemos la supresión de los incentivos en nuestra opinión los incentivos realmente no se abonan por cumplimiento de objetivos

así ha sido en el pasado y por lo tanto podría ser así también en el futuro lo que proponemos con nuestra enmienda es prohibirlos por ley no recuerdo tampoco que en la ponencia se me dieran razones suficientes para definitivamente poder retirar esta enmienda y por ello

en el pleno de hoy en relación a la enmienda número doce lo que planteamos es que los cargos públicos

no puedan compatibilizar su actividad con la de miembro electo de las juntas generales de los territorios históricos ni con la de alcalde ni con la de

o que tenga dedicación exclusiva en su corporación digamos que esta enmienda se sitúa entre la enmienda planteada

original mantenemos también porque pensamos que los cargos públicos tienen que dedicarse a su desempeño y al trabajo

junteros o concejales de localidades con un número de habitantes bastante elevado

ser cargos públicos la enmienda número trece hace referencia a las prohibiciones posteriores al cese como cargo público proponemos ser también más exigentes se dice que quienes desempeñen cargos públicos

según la normativa específica durante los dos años siguientes a la fecha de su cese no podrán prestar ningún tipo de servicio ni mantener relación laboral o mercantil con las empresas sociedades

es un avance nosotros lo que proponemos es que en lugar de ser dos años sean cinco efectivamente se nos dirá que cinco son demasiados

es comprensible es debatible nosotros lo que proponemos es ampliar de dos a cinco años y cosa parecida en relación a la enmienda número catorce se propone aumentar a cinco años la declaración responsable ante la oficina de conflicto de intereses en lugar

propuestos a través de la enmienda número catorce y con la enmienda número quince en relación a la declaración de actividades se propone aumentar a cinco años la obligación de efectuar declaración de las actividades

en lugar de los dos años propuestos y con la enmienda número dieciséis se propone aumentar a cinco años la obligación de realizar declaración de actividades privadas que vayan a realizar tras su cese en lugar de los dos años propuestos y

hacen referencia a las limitaciones patrimoniales en participaciones societarias también para exigir o plantear mayor exigencia la enmienda número diecisiete se propone reducir al cinco por ciento las participaciones directas o indirectas en empresas que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público en lugar del diez por ciento planteado y con la enmienda número dieciocho

en las sociedades mercantiles y la referencia al diez por ciento incluido en el proyecto se bajaría también al cinco por ciento en consonancia con la enmienda

en relación a la enmienda número veinte lo que se propone es aumentar el plazo máximo de prohibición de contratar también de dos a cinco años

y finalmente las enmiendas veintiuno y veintidós

proponen también incrementar el número de años para que en lugar de prescribir a los tres años prescriban a los cinco en fin algunas enmiendas digamos que son más importantes que otras algunas son más de detalle

pero en todo caso lo que pretendemos con todas ellas es mejorar la ley elevar el nivel de exigencia y las incompatibilidades al cargo público proponemos también limitar el sueldo al sueldo de un viceconsejero suprimir por ley los incentivos y prohibir que sean cargos públicos los punteros los alcaldes y los concejales de municipios de más

que la ley pudiera afectar también a los cargos públicos de las diputaciones forales cosa que evidentemente no podrá ser pero que espero que pueda ser en el futuro
más o menos inmediato nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

con respecto a su enmienda relacionada con los territorios históricos y los ayuntamientos como ya hemos debatido en más profundidad la enmienda

transaccional entre el grupo popular y nacionalistas vascos me va a permitir que no vaya

además de que su enmienda como usted mismo reconocía incumple la legalidad vigente y como comprenderá este parlamento lo que no puede hacer es ir contra sus propios

inspiradores de la ley del código de conducta del cargo público lo que décimos es que el cargo público fomentará el uso del euskera creo que en un país

lo más lógico y creo que ahí ha habido un amplio consenso

y se tuvo su debate en su momento con respecto a la enmienda en la que usted quiere establecer el plazo

para no intervenir en asuntos que afecte a empresas sociedades o entidades en las que ha tenido parte el cargo

perfecta razón de ser la explicación que he querido dar al principio de este debate queremos más controles en la política

pero también queremos que sea un ejercicio de puertas abiertas es decir que cualquier ciudadano pueda dar el paso del compromiso público y ejercer tareas de gobierno

podemos correr el riesgo en que nuestros gobiernos se conviertan en gobiernos de funcionarios y yo me niego a eso yo quiero que cualquier ciudadano pueda ejercer la política que es un noble oficio a pesar de los tiempos que corren y que además pueda volver sin una especial penosidad a su puesto de trabajo anterior a su actividad anterior

que podamos hacerlo por lo tanto creo que dos años es suficiente plazo y además en derecho comparado es lo que está dos años en cuanto al salario

no me acuerdo exactamente en qué ley pero creo que se establece por ley que nadie puede cobrar más en el sector público que un viceconsejero por lo tanto eso está ya marcado en una ley y debatía usted sobre la cuestión de los incentivos

una redacción que permiten en casos excepcionales y estoy pensando más en el ámbito del sector

donde se hace necesario para eso se creó además para eso se crearon algunas sociedades públicas en el gobierno vasco para competir de una manera más efectiva para imbricarse más en el sector industrial y económico vasco

requiere también a veces de fichar personas con capacidades para poder ayudar a conseguir que nuestra economía

se deja esa cláusula ahí pero nada más en cuanto a la rebaja que hace usted con el tema

me parece más coherente la posición de eh bildu que es o no estas o estas y vuelvo a defender el texto de la ponencia creo que es muy claro no permite

con la exclusividad en el cargo es decir si tu eres miembro del gobierno en algún cargo del gobierno y tienes además dedicación exclusiva en el ayuntamiento bien sea parcial fija o exclusiva es incompatible por lo tanto los casos que quedan son contados y que pueden ser perfectamente compatibles con la tarea del

creemos en no establecer una especial penosidad con el plazo de los cinco años que usted señala en otros apartados eskerrik asko mendia andrea mintegi andrea zurea da hitza

los incentivos sabe usted que son perfectamente

de los directivos de los entes públicos derecho privado y de las sociedades públicas

de esta ley están incluidos los directivos públicos profesionales y el régimen retributivo de los mismos contempla los incentivos pues no vemos

que usted plantea los directivos tienen que cumplir unos objetivos y en función de eso

existen los incentivos respecto a la compatibilidad con los cargos selectivos ya hemos manifestado nuestros argumentos en la enmienda de bildu y los mantenemos y respecto de las prohibiciones posteriores

sentido que plantea lo mismo décimos respecto a la declaración de actividades que tienen que hacer los cargos públicos

y respecto a la limitación del diez por ciento en participaciones societarias

sí gracias presidenta de manera muy breve en relación al ámbito de aplicación

que emana de este parlamento pueda afectar a los cargos

esto no puede ser posible la distribución de competencias es la que es a día de hoy y la legalidad vigente también

pero en todo caso en fin no hace falta que ustedes voten a favor de esta enmienda en relación a los derechos lingüísticos de los ciudadanos

yo creo que es comprensible que a un cargo público se le exija garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos que es la parte del artículo que nosotros mantenemos es decir todo cargo público lo que tiene que hacer es garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos claro aquí lo que se propone y lo que se añade además debe prestar especial atención al impulso de la normalización del euskera fomentando su uso y digo yo por qué y dice laura mintegi la señora mintegi dice no es que a usted

si puede estar muy bien que aquellos cargos públicos que lo deseen

e impulsen el uso del euskera de la manera que ellos consideren por lo tanto no es que no me guste no es que no quiera que esto lo hagan los cargos públicos lo que digo es que a los cargos públicos no se les puede exigir esta función

evidentemente pero de ahí a exigirles además que tienen que tener como una de sus labores el impulso o el fomento del euskera no esto ya digamos que es voluntario pero no es que no me guste a mí me puede gustar personalmente pero lo que no pretendo es imponerlo

esa labor eso evidentemente se llama imposición no voy a entrar tampoco en relación a los años evidentemente a ustedes les parece bien dos

bueno quizá podríamos haber llegado a un punto intermedio

en relación a que la retribución máxima sea la de un viceconsejero del gobierno vasco si esto lo dice la legalidad vigente a mí no me parece mal que esto pudiera haber sido incorporado también en esta ley que es lo que nosotros proponíamos y en relación a los incentivos claro yo

la necesidad que a veces surge en el sector público de atraer a los mejores a personas que son muy competentes para que realicen esa

y entonces usted reivindica los incentivos pues bien yo creo que eso no son incentivos claro ese es el problema eso será otra cosa por eso yo decía en mi justificación que realmente o muchas veces al menos no se abonan por cumplimiento de objetivos sino que terminan siendo un sobresueldo y entonces es lo que nosotros queríamos denunciar eliminación de incentivos igual se podía llamar de otra forma pero en muchos casos no son incentivos no se les abona una cantidad superior por haber cumplido una serie de objetivos

es inferior claro es distinto entonces ya no estamos hablando de incentivos y

todas las enmiendas también esta de que no puedan compatibilizar su actividad con la de miembro electo de las juntas generales de los territorios históricos ni con la de alcalde ni con la de concejal

o que tenga dedicación exclusiva en su corporación digamos que es un punto intermedio como decía antes entre el texto original y la enmienda de eh bildu

también nos parece correcta nos parece perfectamente razonable nosotros lo que proponíamos era esta que digamos ha quedado un poco en medio de ambas propuestas en fin nada más un placer

muy brevemente mire además de que el tope del sueldo está fijado en la legislación vigente

ninguna persona de la administración vasca es decir de los cargos del gobierno y de muchos de su sector público superan eso

y además se han ido reduciendo se deja la posibilidad de su existencia porque en algunas empresas públicas en algunos sectores públicos trabajar por objetivos y además las personas que van a esas empresas a esas direcciones están acostumbradas a trabajar así por objetivos a diferencia de otros puestos que no tienen la misma naturaleza nada más y muchas gracias

voy a ser muy breve porque creo que sobre esta cuestión ya hemos

a los ayuntamientos y tratando de también de enlazar con un argumento que he dado en mi segundo turno cuando se debatía el tema de los territorios históricos

y por lo tanto la constitución plasma los principios de jerarquía y de coordinación

el gobierno vasco su lehendakari son los que ordenan el tráfico administrativo en la comunidad autónoma vasca y por lo tanto esta y las diputaciones y los ayuntamientos en este caso tienen esa faceta de administración y por lo tanto

tiene la capacidad de tratar de poner un suelo común ético en este caso a todos los cargos públicos que trabajamos

de gestión pública por lo tanto sería establecer unos principios básicos de funcionamiento aplicables a todos los cargos y eso entronca perfectamente con el estatuto de autonomía

básicas estatales con esta disposición adicional segunda estamos convencidos que no incurrimos en ningún exceso que es correcta y que entra perfectamente en coordinación con la ley estatal recientemente aprobada con la legislación que ya teníamos y que no se tiene por qué suscitar ningún conflicto entre los diferentes cargos era solo esto el apunte que quería hacer porque creo que sobre el fondo ya hemos debatido

emendatu dituen artikuluak del texto del dictamen los enmendados por upyd votamos seguido bozkatu dezakegu

iraunkor berria gehitzea hori bozkatuko dugu vale cuál separo artículo

trece y el artículo dieciséis ya se han votado y en todo caso

entiendo que habría que votar de manera separada sí xedapen iraunkor berria

de eaj pnv porque las del pp han sido retiradas ehun eta berrogeita seia

gracias presidenta lehendakari señorías la contratación pública no puede interpretarse como un instrumento ajeno al marco jurídico general

por tanto y más si cabe en este momento socio económico la licitación adjudicación y ejecución de los contratos públicos

por lo que atendiendo al interés público además de la mejor propuesta económica deberá buscar la oferta con mayores beneficios sociales

por lo tanto la contratación pública posee una notable incidencia en el mercado y en el entorno debido a su enorme importancia cuantitativa y cualitativa

en la economía se calcula que aproximadamente o real el dieciocho por ciento de la contratación pública en europa el dieciocho por ciento del producto interior bruto

es algo más que notable y también desde un punto de vista cualitativo porque es una actividad ejemplarizante que sirve de referencia y demás

existente sobre la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos es abundantísima es abundantísima y no es de última hora

reproduce la misma argumentación que acuerdos que se han adoptado en esta cámara precisamente a favor de la inclusión de cláusulas sociales el gobierno despachaba diciendo

oportuno puesto que hay una inseguridad jurídica en la materia y por lo tanto tanto en el acuerdo del diecisiete de octubre que le instaba y le emplazaba a redactar un pliego

de la misma manera se despacha hoy con el criterio de que

no corresponde tomar en consideración esta propuesta tengo que decirles que desconozco en principio con qué título competencial los postulantes plantean este tipo de iniciativa

porque en primer lugar concuerda con los postulados que el partido socialista viene defendiendo y en segundo lugar porque no tenemos la más mínima duda de que el acerbo jurídico

y como digo hay abundante

que abona la tesis de que se pueden incluir cláusulas sociales con diferentes planteamientos en las licitaciones públicas pero me voy a permitir remontarme nada más y nada menos que a la conferencia general de la oit en junio de mil novecientos cuarenta y nueve se acordó el siguiente convenio ya entonces

los contratos a los cuales se aplique el presente convenio deberán contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios jornada y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada en la misma región a por medio de un contrato colectivo

y de trabajadores b por medio de laudo arbitral cien por medio de la legislación nacional

deberá tomar medidas apropiadas tales como la publicación de anuncios relativos a los pliegos de condiciones o cualesquiera otras que permitan a los postores conocer los términos que las cláusulas el artículo

por las autoridades públicas se deberán aplicar sanciones adecuadas tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente

o cualquier otra que se estime pertinente a fin de que los trabajadores interesados puedan obtener los salarios a que tengan derecho bueno esto es en mil novecientos cuarenta y seis aunque españa entró en la oit en mila bederatziehun eta hemeretzi en ese periodo no estaba hasta el año cincuenta y seis

los tratados internacionales forman parte del derecho interno además existe otra mucha normativa que si tengo ocasión también reproduciré pero debo decir en primer lugar que la razón por la cual esta iniciativa se trae hoy aquí es porque hasta ahora el gobierno ha resistido

en orden a incluir estas cláusulas sociales que por lo demás es público y notorio que en fin que son admisibles en la contratación pública pero señaladamente

a los convenios territoriales el gobierno se ampara en un planteamiento absolutamente evasivo

estaban basados en directivas que han sido derogadas por la más reciente

que deja sin lugar a dudas en otros debates que he tenido ocasión de leer los párrafos

que la sujeción de los contratos públicos a las condiciones de trabajo del lugar

el gobierno si no lo hace es porque realmente no responde

que afirma respecto de lo que es la defensa de la negociación colectiva que como fruto genuino de la misma que son los convenios

en los últimos días semanas y meses que obras emblemáticas obras emblemáticas

en nuestro territorio están siendo objeto de importantes denuncias por parte de los representantes de los trabajadores sobre las condiciones de

y por supuesto con vulneración total y flagrante de las condiciones de trabajo establecidas por los convenios como digo

en este parlamento el criterio desfavorable del gobierno no plantea absolutamente objeción alguna en esta cuestión en cuestiones de competencia por lo tanto podía deducirse que en principio no hay obstáculo aunque yo como digo no termino de encontrar el acomodo pero no quiere decir que no existan instrumentos como se planteaba el diecisiete de octubre que al hilo de la ley de contratos del sector público

todas esas condiciones el artículo ochenta y dos del estatuto de los trabajadores deja inequívocamente claro

que están todas las empresas y trabajadores concernidos en su ámbito de aplicación obligados

y sujetos a los convenios cabe por lo tanto interpretar que pueda haber espacios puede haber auténticos guantánamos donde

pueda ser sustraída entendemos que no una iniciativa popular no puede por menos que ser acogida con independencia que se esté de acuerdo o no en todos sus contenidos

asume y toma en consideración esta iniciativa para que sea posteriormente tramitada discutida analizada y entiendo que enriquecida si es que realmente

existe capacidad y competencia para legislar en la materia

el gobierno tiene instrumentos como digo directivas recientes y nada más y nada menos que convenios de la oit que se pierden en la noche de los tiempos

que no se corresponde con lo que se afirma porque la defensa de la negociación colectiva tiene que reflejarse efectivamente en actos y acciones concretas y una de ellas es la obligatoriedad de su cumplimiento nada más y nada menos que en los contratos públicos sean de obra sean de suministro sean de servicios esa sujeción es indiscutible

obligación deben de concurrir todos los postores todos los licitadores sabiendo

efectivamente el sometimiento a esas condiciones de forma pública y notoria de manera que no quepan fraudes de ley como están ocurriendo acomodando a trabajadores desplazados y sujetándolos a convenios

en otros lugares como tengo tiempo puedo decir que existe una directiva

los estados miembros velarán porque cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral

garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo relativas a las materias

por disposiciones legales por convenios colectivos es que realmente como digo es abrumadora la normativa

pero realmente no es un problema de inseguridad jurídica es como digo un problema de voluntad política y por lo tanto nosotros entendiendo que este debate

que no terminará hasta que finalmente esto sea un hecho y todos aquellos actores económicos que quieran concurrir a la contratación pública

a las mismas condiciones a las que están las empresas locales que tienen obligación de cumplir también con esos convenios porque realmente el argumento de la competencia es un argumento realmente

a alguien se le ocurre pensar que una empresa foránea pudiera alegar en el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo que no le es aplicable nuestra normativa en prevención de riesgos laborales porque tiene una de origen no no se le ocurriría a nadie pensarlo lo mismo con el resto de condiciones de trabajo jornadas salarios etcétera

y muchas más que harían esta intervención prolija y farragosa es por lo que nosotros tomamos en consideración esta iniciativa nada más y muchas gracias

euskal agintaritzak autoridad vasca de la competencia delakoak

que nada quiero señalar que a upyd le habría gustado que esta iniciativa legislativa popular hubiera podido ser defendida en este pleno por los propios proponentes esperamos en todo caso consecuencia por cierto de una iniciativa de upyd que esto pueda ser posible en el futuro de tal forma que la próxima iniciativa legislativa popular

por los propios proponentes y no solo que pueda ser defendida en pleno por los proponentes sino que los propios proponentes puedan participar

para que puedan fijar su posición en relación a las enmiendas y a las propuestas de los partidos políticos no deberíamos tener miedo al debate abierto

promotora pudiera estar presente en la ponencia y en la comisión estas medidas

no solo ayudarían a que los ciudadanos recuperen la confianza en la política sino sobre todo a la propia regeneración del sistema y a un funcionamiento más democrático y mejor

entrando en la cuestión paso a explicar digamos casi telegráficamente las razones por las cuales hemos considerado que había que votar a favor de la toma en consideración de esta ilp

lo cual no significa que tengan razón en todo cuanto se propone ni que en todo

pero sí que es un número lo suficientemente relevante como para que deba tomarse en consideración y la debatamos a fondo después porque el contenido de esta ilp

a la que nos han traído algunos dirigentes políticos como consecuencia de los recortes sociales como consecuencia de la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores como consecuencia del incremento del paro y del desempleo como consecuencia del incremento de la temporalidad y la precariedad y como consecuencia de la multiplicación

y que debemos tratar de corregir como consecuencia de todo esto surge esta ilp y evidentemente nuestra obligación es votar a favor

si ni siquiera quisiéramos debatir sobre los asuntos que plantea esta ilp y sobre como resolver los problemas existentes qué iban a pensar de nosotros los ciudadanos por tanto

y que cada partido político plantee vía enmiendas los cambios que consideren necesarios para corregir esta ilp en lo que pueda ser corregida y para perfeccionarla

la iniciativa toca una cuestión sensible los derechos laborales y sociales en las subcontratas de las administraciones públicas y plantea que se obligue a las administraciones a respetar unos mínimos laborales y sociales cuando deciden subcontratar servicios pretende establecer una serie de requisitos de obligado cumplimiento

de concesión de obras públicas de gestión de los servicios públicos y de servicios de los que formen parte el sector público de euskadi

como que se respeten las condiciones del convenio provincial de ámbito más inferior del sector y de subrogar a las personas trabajadoras cuando se produzca un cambio de empresa o esa empresa contratista subcontrate su actividad con terceros

para las empresas que incumplan los requisitos establecidos todos estos son asuntos ciertamente relevantes todos estos son asuntos interesantes que deben ser debatidos que queremos que se debatan la ilp toca estas cuestiones sensibles de un modo que nosotros consideramos

pero ya digo esto es corregible habrá que presentar enmiendas para corregir lo que no respete la legalidad vigente o pueda provocar determinadas disfunciones y para corregir todo aquello que sea mejorable además la ilp no toca determinadas cuestiones que nosotros consideramos y también ahí deberán ser útiles las enmiendas que presentemos los distintos grupos en todo caso nos parece interesante que desde las administraciones públicas se trate de favorecer que las empresas tengan un régimen laboral decente digno nos parece interesantes que podamos hablar que debatamos sobre la ilp y tratemos entre todos de mejorarla y porque como decía al principio su contenido es social y trata de poner freno a determinados abusos y determinadas injusticias que deben ser corregidas

de la inclusión de determinadas cláusulas en la contratación pública cosa que me parece perfectamente razonable horregatik

no es la primera vez que hablamos en este pleno de cláusulas sociales

y como hemos dicho en otras ocasiones la contratación pública creemos que puede ser un instrumento al servicio

fines o políticas públicas es decir puede ser una técnica para conseguir objetivos de política social que se estimen de interés general estos criterios

objeto de la iniciativa de cumplimiento de una serie de normativas laborales viene siendo admitidos y fomentados por las instituciones

que prevé mecanismos para la introducción en la contratación pública de consideraciones de tipo social también pueden arbitrarse y utilizarse medios dirigidos a asegurar el cumplimiento de las condiciones laborales en las empresas adjudicatarias de los contratos del sector público y en este sentido ha supuesto un hito importante la normativa comunitaria en relación a las cláusulas sociales la directiva dos mil catorce barra veinticuatro del parlamento europeo y de consejo europeo

sobre contratación pública que supone un considerable avance en materia de cláusulas sociales despejando dudas existentes y abriendo nuevas posibilidades

los contratos reservados a empresas de inserción se consagra de forma inequívoca la legalidad de los criterios sociales de adjudicación por ejemplo y con respecto a la cuestión objeto de esta iniciativa esta directiva ofrece garantía jurídica inequívoca de legalidad al exigir el cumplimiento de los convenios colectivos y garantizar unos mínimos laborales y salariales y lo hace en el artículo dieciocho cuando se insta a los estados miembros a tomar las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos públicos que los operadores económicos

lo hace y no me voy a extender en los considerandos treinta y siete treinta y nueve y ciento cinco

se contempla el texto refundido de la ley de contratos públicos aprobado por real decreto legislativo tres barra dos mil once contiene dentro de su articulado mecanismos para introducir en la contratación cláusulas sociales en la iniciativa que hoy se nos presenta lo que se solicita es que todos aquellos contratos regulados por los artículos seis siete

concretamente lo que pretende es una regulación de las cláusulas referidas a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas las referidas a la subcontratación y se establece también las consecuencias del incumplimiento señalando que podría dar lugar a la resolución del contrato

en todo lo relativo a las condiciones laborales de jornadas salarios seguridad y salud en el trabajo tanto en las empresas con las que directamente contrate como en aquellas que estas últimas subcontraten debe primar aquellas que no hayan tenido sanciones y establecer mecanismos de control en las contrataciones de obra de todo tipo de servicios públicos

pero debe hacerse dentro de los términos establecidos en la normativa vigente tanto a nivel nacional como a nivel comunitario en lo relativo a materia laboral

la iniciativa legislativa popular hoy objeto de debate se mueve en los mismos parámetros como se ha dicho aquí

cuatro barra dos mil trece que se encuentra recurrida ante el tribunal superior de justicia

y además también puede haber dudas sobre la posible conculcación de la legalidad laboral vigente y es claro como hemos dicho en otras ocasiones que no se puede primar aquellas empresas

que no cumplan la legalidad o en sentido contrario penalizar aquellas empresas que lo único que hacen es cumplir la ley nos hemos abstenido en esta iniciativa legislativa popular

es una iniciativa legislativa popular es por lo que nos hemos abstenido porque lo que se viene aquí a debatir es si nos parece correcto el contenido de la iniciativa o no nos parece correcto el contenido de la iniciativa y el contenido de la iniciativa es dudoso porque ya digo que puede dudas de legalidad y además ese contenido es el mismo que está siendo objeto de recurso y habría que esperar a ver la resolución del mismo en cualquier caso

nos va a permitir la introducción mediante el mecanismo de las enmiendas finalmente el objetivo perseguido con el que sí estamos de acuerdo que es la posibilidad de introducir estas cláusulas es por lo que desde aquí digo que

conseguir el objetivo pero siempre respetando la legalidad vigente y los principios de competencia nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

en la gestión de lo público en la gestión de los intereses de la comunidad los ciudadanos demandan rigor y responsabilidad a sus gobernantes y a nadie de los que estamos aquí se nos escapa que el gobierno responde también políticamente ante este parlamento y en más de una ocasión saben ustedes que me he preguntado qué tipo de responsabilidad

al gobierno en caso de que el gobierno desatendiera todos los informes jurídicos que dispone y que cuestionan la legalidad

iniciativa no puede ser que la contratación administrativa quiera utilizarse para regular las condiciones laborales saltándose la normativa laboral vigente eso es algo que no se puede hacer claro que se pueden incluir las cláusulas sociales

pero esas cláusulas deben respetar en todo caso el derecho de los estados y el derecho también de la unión estamos de acuerdo en que no nos gusta la reforma laboral pero tampoco se trata de judicializar la contratación de nuestra administración porque eso conllevaría el riesgo de tener toda una administración paralizada y seguro que ustedes comparten conmigo que eso no nos lo podemos permitir dicho lo anterior

de presentar enmiendas y de trabajar en la ponencia que se constituya para mejorar el texto de la iniciativa original y aportar soluciones de cara a dotar de seguridad jurídica a los derechos de los y las trabajadoras

ha sido pionero en este país porque hace tiempo que nosotros sabemos que la contratación pública sirve también para impulsar otro tipo de políticas públicas hemos defendido y hemos trabajado para que cualquier actividad laboral se realice con las mayores garantías y las mejores condiciones laborales para todos los y las trabajadoras ahí estamos ahí seguimos estando y

tenemos sobrada experiencia en el año dos mil seis el gobierno del lehendakari ibarretxe implantó cláusulas sociales a través de las instrucciones de contratación y recientemente

ha aprobado sus instrucciones de contratación para garantizar entre otros aspectos el mantenimiento de condiciones laborales de los trabajadores con estricto respeto al marco normativo vigente respetamos profundamente

la iniciativa legislativa popular de igual manera que respetamos profundamente a los trescientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y seis ciudadanos y ciudadanas vascas

y responsabilidad finalizo reiterando el firme compromiso de nuestro grupo en trabajar para hacer nuestras aportaciones y mejorar el texto

muchas gracias señora presidenta tomo la palabra para defender la proposición de ley presentada por el partido nacionalista vasco y el partido socialista en favor de la modificación

que está ocasionando la actual ley del suelo y urbanismo en ciertos municipios vascos en concreto en materia de núcleos rurales hicimos diversas solicitudes de comparecencia

del parlamento vasco entre ellos solicitamos la comparecencia de doña miren

de administración y planificación territorial del gobierno vasco

donde tuvimos conocimiento que de los doscientos cincuenta y uno municipios que componen la comunidad autónoma vasca únicamente cincuenta y seis habían cumplido con la obligatoriedad de adaptar sus planes generales o normas subsidiarias a la ley vasca del suelo y que otros sesenta y cinco municipios son los que se encuentran

es decir un total del cuarenta y ocho coma veintiuno por ciento de los municipios vascos

en trámites de cumplir con la voluntad del legislador mientras el cincuenta y uno coma setenta y nueve por ciento es decir ciento treinta municipios

en los plazos establecidos que como todos conocemos era de ocho años desde la entrada en vigor de la ley y esos ocho años vencen el próximo veinte de septiembre de dos mil catorce

ese es el motivo señorías por el cual presentamos esta propuesta de

para debatir de forma urgente pero continuando con la mencionada comparecencia de la viceconsejera de administración y planificación territorial del gobierno vasco un servidor le preguntó si está entre los planes del departamento la revisión y modificación de la ley del suelo y urbanismo para solventar los diversos problemas que había generado en los municipios y a su vez

la señora iriarte nos contestó que podía ser iniciativa del gobierno vasco la modificación de la ley del suelo para ampliar el plazo de adaptación pero que no tenían previsto esa previsión

legislativo en concreto dijo que en esta legislatura no se iba a acometer y añadió es una pena que esta cuestión esté así pero el gobierno vasco desde la comisión de ordenación del territorio va a recordar a los municipios que no hayan adaptado su normativa que se adecuen a la ley para el partido socialista

viceconsejera que ante una situación de inseguridad jurídica en la que se iban a encontrar aquellos municipios vascos que no tuvieron un plan general o norma subsidiaria adaptada en el próximo veinte de septiembre al colocarse en una situación al margen de la legalidad la señora viceconsejera simplemente respondía diciendo que desde el departamento solo se iba a hacer un recordatorio en la comisión de ordenación al territorio tras esta contestación y porque nos parece preocupante como he dicho anteriormente la situación de inseguridad jurídica en la que se podrían llegar a encontrar diversos municipios vascos

para su debate en pleno por el procedimiento de urgencia sobre la modificación de la ley del suelo y urbanismo donde instamos al gobierno a las tres diputaciones vascas

en aquellos aspectos que afectan negativamente a los distintos municipios vascos

no de ley porque creemos que así y así se ha demostrado que la ley dos barra dos mil seis de treinta de junio de suelo y urbanismo debe ser revisada y modificada

del apartado uno de su disposición transitoria segunda relativa al plazo que tienen los municipios vascos para la adaptación de sus normativas urbanísticas

el trece de abril del dos mil once en relación a la acción política en materia de vivienda y regeneración

y por el cual el partido socialista en mayo de dos mil doce ya presentó una proposición de ley para su modificación pero que lamentablemente

pues se quedó sin su tramitación plenaria por eso cuando el partido nacionalista vasco nos trasladó que el gobierno estaba en disposición de revisar la ley nos alegró

rectificar y nosotros como desde el partido socialista estamos satisfechos que el gobierno haya dado el visto bueno a esta proposición de ley y por eso

con el partido nacionalista vasco en firmar esta proposición no de ley y retirar la proposición no de ley presentada por el partido socialista

aunque creemos que este proyecto de ley es insuficiente

en la que se podrían llegar a encontrar los municipios vascos a partir del veinte de septiembre si no se realiza esta modificación pero consideramos como he dicho que es insuficiente

y ya han salido y todo el mundo conocemos por eso nosotros volvemos digamos que ya hemos vuelto a registrar la proposición no de ley solicitando

para estudiar entre ellas cuáles son los diferentes aspectos de la ley que pueden ser afectados que afectan a los municipios vascos y que puedan ser modificados muchas gracias

este problema vino originado por la situación de inseguridad jurídica en la que se quedan las relaciones de los ciudadanos con la administración urbanística municipal

el ciudadano señorías tiene derecho a conocer en todo momento cuál es la normativa urbanística aplicable a una parcela a un terreno

en el mismo y cuanto de ello y los usos permitidos o prohibidos

el ciudadano demanda certeza y confianza en las relaciones civiles y mercantiles en las derivadas del tráfico inmobiliario

no se puede garantizar en muchos casos por cuanto se producen contradicciones entre normas del mismo rango en los casos en que hay contradicción entre las determinaciones derivadas de la ley del suelo y las contenidas en los planes generales y normas subsidiarias no adaptadas al mismo

deberán ser adaptados a su determinación en el plazo máximo de ocho años

como ya se ha dicho de los doscientos cincuenta y uno municipios que la comunidad autónoma

escasamente una cincuentena entre los municipios que no han adaptado

laudio y amurrio en araba bilbao getxo barakaldo basauri santurtzi o sestao por ejemplo en bizkaia

consecuentemente podemos entender que se ha producido un incumplimiento generalizado de este mandato legal mandato que se dirige al municipio y solamente a los municipios en el que no puede subrogarse ni las diputaciones ni el propio gobierno vasco seguramente existen razones que explican el actual estado de la cuestión tales como el elevado coste económico de los trabajos

por la que estamos atravesando que aconsejan destinar estos escasos recursos a otras necesidades municipales seguramente más apremiantes

por no hablar del desgaste político que conlleva la elaboración y aprobación de los planes urbanísticos estas razones sirven para explicar las situaciones en las que nos encontramos pero no resuelven el problema señorías el problema sigue estando ahí

concretamente proponemos ampliar el plazo siete años más y además facultar al gobierno para que hipotéticamente una vez agotado este plazo

con ello se arbitra un procedimiento más ágil que hipotéticamente el mecanismo

y se posibilita una mejor adaptación a la situación de cada municipio

con plumas ajenas porque para resolver este problema nuestro grupo propuso hace tres meses otra cosa es el problema de comunicación interna que existe en su grupo digo que para resolver este problema se propuso hace tres meses a los restantes grupos que estamos trabajando en el seno de la ponencia de la producción de la ley de vivienda se produjo como digo tramitar una iniciativa de idéntico contenido e

de la proposición de ley de vivienda pero a la vista de la marcha de los trabajos de la ponencia

de resolver este problema que se planteará en el mes de septiembre y por eso hemos optado por esa otra vía la del específico procedimiento de modificación de la ley del suelo procedimiento que esperamos sea apoyado

nuestro grupo va a votar a favor de la toma en consideración de la modificación de la ley del suelo como no podía ser de otra manera dijera lo que dijera el articulado que se propone porque peor ley del suelo que la que tenemos en esta comunidad autónoma desde hace muchos años no se puede tener nosotros discrepamos

y discrepamos porque nosotros estaríamos dispuestos a darle tiempo indefinido a los ayuntamientos para adaptarse a esta ley tiempo indefinido porque como ha señalado

la creó desde el minuto uno porque no es una ley que se hizo pensando en los municipios para nada por todos los grupos que la apoyaron y que creo recordar

de una forma importante el proyecto que ya era malo que venía del propio gobierno vasco conformado por pnv ea e izquierda unida en aquel momento y ly también aprobada por aralar por lo tanto

de todos los que estamos en esta cámara el señor maneiro creo que no estaba pero los únicos que dijimos que era una barbaridad de ley creo recordar que fuimos nosotros y nos quedamos solos

que el partido nacionalista vasco nos diga que se está produciendo un incumplimiento legal y es verdad que se está produciendo

que se siga produciendo y vamos a alargar más el plazo para que se produzca y este problema

dirigido por el partido socialista y por el señor lópez incumplió su compromiso de traer una modificación de la ley del suelo y este gobierno

parece que tampoco va a traer el proyecto de ley de modificación del suelo de verdad que necesita esta comunidad autónoma repito vamos a votar a favor de la toma en consideración

no estamos de acuerdo con lo que se plantea pero sobre todo con lo que no estamos de acuerdo es que el plazo de adaptación se delegue en el consejero o consejera

nos parece inconcebible que se diga desde una ley

un consejero o consejera de turno quien alargue o acorte

de adaptación a la ley entendemos que es una barbaridad jurídica que eso no puede ser pero le repito que nosotros en el trámite de enmiendas estaremos dispuestos incluso
a plantear que no se adapten nunca muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna aurkako txandan

muchas gracias señora presidenta señor aldaiturriaga no es mi intención vestir con plumas de nadie

una iniciativa de este tipo qué es lo que ha hecho durante este tiempo el gobierno por qué no ha presentado ningún proyecto de ley para modificar la ley del suelo

dijo que no era intención que no estaba en sus planes por lo tanto si ustedes hace tres meses ya planteaban esta modificación por qué el gobierno dijo que no

el día trece de abril de dos mil once un pleno monográfico en este pleno

donde hubo una serie de resoluciones que se aprobaron y a raíz de esas resoluciones el partido socialista el cuatro de mayo de dos mil doce presentó una proposición de ley para modificar la ley del suelo

igual que ahora viene el partido nacionalista vasco que era más rápido para poder realizar esa modificación

porque se convocaron las elecciones y por lo tanto ya no se volvió a esta cámara a trabajar no diga

la ley señor maeztu usted dice que las leyes son para cumplirlas claro

pero qué hacemos entonces en esta cámara si estamos en contra de algún aspecto de cualquiera de ellas no tenemos la voluntad o la capacidad como parlamentarios o como cámara parlamentaria

que ustedes han presentado una proposición de ley de modificación de la ley cuatro barra dos mil once de modificación de la ley para la garantía de ingresos

qué pasa que usted sí está legitimado a presentar aquellas modificaciones de ley que considera oportunas y el resto de los parlamentarios no

las leyes a su antojo lo que les parece pero el resto de los parlamentarios no pueden opinar que haya aspectos de ley que se tienen que cambiar el partido socialista considera coincidimos con el partido popular que hay varios aspectos de la ley que hay que cambiar no solo esa disposición transitoria sino muchísimos más pero creemos que la situación de inseguridad jurídica y le vuelvo a decir que aunque

y los municipios todavía no adapten las normas subsidiarias o los planes generales a la ley del suelo

se tiene que cumplir pero puede suceder que un alcalde pueda estar concediendo algún tipo de licencia urbanística

por desconocimiento o por no aplicación de la ley por lo tanto la mejor solución para que no haya ninguna inseguridad y no

ilegalidad es dar el plazo a los ayuntamientos para ampliación de plazo

y comparto con usted y nos tendrá con usted si plantea alguna iniciativa en el siguiente presupuesto en el departamento para contemplar cualquier subvención para

a la ley del suelo actual pero creo que

que debería de estar en la disposición transitoria creo que está fuera de lugar eskerrik asko zaballos jauna

dejó de decir la viceconsejera en la comisión porque ahí están las actas y

la viceconsejera no dijo que suponía modificación de la ley del suelo en el aspecto relativo a la adaptación a los

digamos marginal para que los sapos y culebras que encerraba el texto salgan aquí en esta mesa

siendo amable en la expresión diremos que es un texto manifiestamente mejorable

el objeto del debate de hoy no es o básicamente si continuamos con la actual situación o todavía

ya sé que para algunos que están anclados en el cuanto peor mejor pues todavía no se han despegado

para nosotros cuanto peor señor maeztu peor le puedo ampliar cuando quiera y lo sabe perfectamente porque hemos tenido fuera de

y muchos de ellos con participación activa de los miembros de su propia coalición por tanto yo creo que no es el momento ni el lugar para reprocharnos cosas al respecto

efectivamente el partido nacionalista vasco es partidario de cumplir la ley pero hasta que se modifican una vez que se modifican habrá que comprar la nueva legalidad poniendo las leyes que se establecen y a partir de ahí se modifican y se cumplen en cualquier caso

es un asunto que afecta como lo he dicho anteriormente

competencia exclusivamente municipal respecto al coste económico es cierto que hay líneas subvencionales

pero insisto en que la competencia es de los municipios y a veces cuando se establecen ayudas o programas de ayudas pues automáticamente algunos nos acusan de estar produciendo duplicidades en la actuación administrativa

maeztu yo no sé si estuvo aquí usted en el día en el que estuvieron los representantes del ayuntamiento de karrantza pero plantearon un caso

municipales del año noventa y dos y las derivadas de la aplicación de la ley del suelo en

por tanto problemas existen otra cosa es que usted no lo quiera ver yo creo que como digo

muchas gracias señora presidenta señor maeztu bienvenido al club

su grupo plantee el cumplimiento de todas y cada una de las leyes que existen y que nos afectan a todos y que todo el mundo tiene que cumplir y no nos vengan planteando el incumplimiento sistemático

nos planteará en esta cámara como usted ha hecho que se cumpla la ley yo estoy de acuerdo bienvenido al club y solo le voy a recordar que la ley

y que no es obligatorio adaptarse mientras no se cumpla ese plazo de ese periodo por lo tanto están cumpliendo la ley y nosotros somos partidarios de que la sigan cumpliendo con un plazo

hay gobiernos que hacen que hacen pero no hacen no hacen el gobierno del señor lópez

el grupo nacionalista vasco sabe hace muchos años que es una ley manifiestamente mejorable como nos han dicho su grupo sabe hace muchos años incluso estando en el gobierno

saben que es manifiestamente mejorable y su grupo cuando estaba en el gobierno

no presentó ningún proyecto de ley de modificación del suelo

dos minutos antes de disolver el parlamento no lo han vuelto a presentar ustedes en esta legislatura como proposición de ley del partido socialista

aquí a todo el mundo dice que es manifiestamente mejorable pero nadie está dispuesto a que lo mejoremos

ya en el siguiente periodo de sesiones para ver si de verdad estamos dispuestos a mejorar esa ley que todo el mundo dice que es manifiestamente mejorable y en cuanto a los núcleos rurales que es lo único que está saliendo de esta ley aquí hubo grupos sobre todo de la izquierda

que ellos sabrán y algún día tendrán que explicar por qué estaban empeñados en fastidiar a los núcleos rurales y este debate lo tuvimos en su día en este parlamento por qué los núcleos rurales tienen que ser cada vez más pequeños y además no tener derecho a ningún servicio y a nada

plantear y empeorar el proyecto de ley que venía del gobierno eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz maeztu jauna zurea da hitza

por partes claro que sí señor zaballos si está en contra de una ley se cambia si ese no es el debate de hoy el problema es que no se está cambiando la ley se está queriendo modificar

de una ley y no sabemos por qué razones cuales son las verdaderas razones de contenido que se tienen para cambiar esa ley cambiar un plazo de ocho a quince años no es cambiar una ley es cambiar el régimen transitorio de esa ley

de cuáles son los contenidos que están hoy ustedes planeando por encima de esa ley que quieren cambiar porque yo me miro la ley y veo la clasificación del suelo es de aplicación directa las determinaciones sobre ordenación estructural de aplicación directa independientemente de

aplicación directa determinaciones sobre ordenación pormenorizada aplicación directa límites máximos y mínimos sobre edificabilidad urbanística aplicación directa

se deben adaptar también a la ley desde el año dos mil seis desde que se aprobó todos los planes de ordenación pormenorizadas se deben adaptar a la ley desde el año dos mil seis

las determinaciones sobre proyectos de gestión y urbanización también deben de estar adaptados a la ley

si se hace a posteriori adaptados a la ley estándares y cuantías mínimas de vivienda de protección pública

tienen que estar adaptados a la ley las equiparaciones terminológicas todas áreas sectores medidas de ejecución edificabilidad

el régimen de realojo también y qué decir que desde el año dos mil ocho

en las plusvalías eso es automático y se aplica automáticamente

del plan general de ese municipio por lo tanto qué es lo que ustedes quieren cambiar de esta ley cuáles son

claro que todo es mejorable pero todo también es empeorable señor

damborenea todo es empeorable y ese es el problema y esa es la preocupación de euskal herria bildu

donde hay partidos que gobiernan en algunos ayuntamientos que quieren cambiar esta ley aunque no dicen dónde pero que podemos ver por ejemplo

que no se podía cambiar puntualmente de esa manera esa ley o en ondarroa donde querían construir quinientos viviendas

esas son las cosas que les molestan a ustedes por eso quieren cambiar la ley pues díganlo

sobre cambiar una ley que dicen que es mejorable y lo único que cambian es la disposición transitoria de esa ley y para acabar

pero si ustedes se leen la ley del suelo y urbanismo del país vasco los núcleos urbanos lo único que hace es definirlo los núcleos rurales perdón son

a la hora de establecer los núcleos rurales ahí esta el debate

que lo único que hace es definir cuales son esos núcleos rurales

los inventarios y ahí se situará ese debate

lo que sí nos preocupa es la afición que tienen muchos a hacerse
en suelos que podían tener un uso agroforestal cada vez mucho menor en este país nada más eskerrik asko maeztu jauna eztabaida